por mucho que este parlamento vaya a ratificar o a proclamar que euskal herria tiene derecho a la autodeterminación por mucho que

el partido nacionalista vasco por mucho que este parlamento lo ratifique no existe ese derecho y por lo tanto lo que aquí se vaya a acordar hoy con el voto favorable de eh bildu y veremos si con el voto favorable del partido nacionalista vasco evidentemente no tendrá ninguna aplicación práctica

políticas que el resto de partidos políticos vayamos a tomar a partir de ahora veremos cuál va a ser la respuesta política del partido popular y del partido socialista de euskadi

en el caso de que el lehendakari hoy vote a favor del derecho a la autodeterminación de euskal herria esto yo creo que debería tener consecuencias políticas inminentes creo que hay algún acuerdo firmado entre distintos grupos si

en fin encontraríamos razones suficientes para elevar nuestra contundencia política y exigir también al resto de partidos políticos que tienen más fuerza que upyd a que tome medidas medidas profundas porque no se puede admitir en todo caso nosotros mañana vamos a preguntarle al lehendakari

cuál es el modelo de estado que usted defiende para ver si conseguimos aclarar qué es lo que usted defiende si defiende un estado federal asimétrico

o si lo que defiende es la independencia para aclararnos para que los ciudadanos si efectivamente el partido nacionalista vasco quiere la independencia ya esa es la ley de claridad que necesitan los ciudadanos vascos ya digo

a la autodeterminación y dónde está esto escrito quién lo dice en que legislación está dónde está recogido

la euskal herria de los siete territorios de los seis de los cuatro de los tres también gipuzkoa y san sebastián también álava tiene derecho a la autodeterminación

solo los pueblos tienen derecho a la autodeterminación los pueblos que ustedes decidan

a la autodeterminación quién decide qué es pueblo cualquier grupo de ciudadanos puede independizarse de una parte del territorio donde residen en fin son preguntas que usted deberán de responder en lugar de

cínicamente por encima de la legalidad vigente por encima de la voluntad de la ciudadanía por encima de la voluntad de la ciudadanía

hay que decir que el derecho a la autodeterminación no existe y que es una absoluta falacia de hecho el derecho a decidir o el derecho a la autodeterminación de los nacionalistas lo que realmente pretende es que haya una parte de los ciudadanos

y ante eso lo que tenemos que recordarle señores nacionalistas es que el modelo territorial del estado lo decidimos el conjunto de los ciudadanos españoles el futuro del país lo decidimos el conjunto de los ciudadanos españoles les guste o no por mucho que ustedes proclamen hoy

el modelo territorial del estado lo decidimos el conjunto de los ciudadanos el derecho a la autodeterminación no está recogido en ninguna constitución

internacional no existe la secesión de una parte de un territorio no está recogido en ningún lugar y por lo tanto

aplicación práctica y obviamente no existe en españa y es contrario a la legalidad vigente y a la propia constitución española por tanto tranquilidad lo que supuestamente se vaya aprobar hoy aquí

ninguna aplicación práctica tampoco hay mucho más que decir ciertamente cuál es nuestra enmienda cuál es la enmienda que nosotros hemos presentado

bien esta enmienda fue la que se aprobó hace algunos meses en el congreso de los diputados con el voto del partido socialista del partido popular y de upyd

nuevamente su apoyo en el caso de que llegará a votarse para que aquí también se diga que bajo ningún concepto una parte de la ciudadanía puede decidir sobre la organización

para que sea firme que ninguna autoridad o poder público tiene derecho a privar a todos o parte de los ciudadanos residentes en su territorio de los derechos y libertades que la constitución española y garantiza para que se señale que un estado social y democrático y de derecho nadie está por encima de la ley y no puede permitirse trocear el cuerpo de la ciudadanía ni redefinir el sujeto de la soberanía nacional para que se afirme que la constitución de mil novecientos setenta y ocho es el marco de convivencia entre los españoles

de la seguridad jurídica y la lealtad institucional que los poderes públicos tenemos la obligación de preservar y para recordar también los artículos uno punto uno uno punto dos de la constitución española que está a día de hoy vigente ya digo esto es lo que se aprobó en el congreso de los diputados hace muy pocos meses y espero que en el caso de que pueda votarse tanto el partido popular como el partido socialista voten a favor de ella gracias

por la advertencia que nos ha lanzado el señor maneiro de qué es lo que teníamos que hacer con el lehendakari no sé si el lehendakari va a votar hoy o no

que le fusilen a usted al amanecer en cualquier caso y fuera bromas bildu nos trae para debate una iniciativa que tiene muy poco que ver

una propuesta que está pensada únicamente en función de determinados intereses en este caso intereses privados del mundo nacionalista y de sus peleas para ver quién tiene la hegemonía en ese campo no es desde luego una iniciativa que tenga por objeto

que no son los que se plantean en esta iniciativa superar la crisis recuperar el empleo y mantener los derechos sociales tiene muy poquito que ver con lo que ustedes nos traen

dar respuesta a los problemas del nacionalismo que hoy como siempre resulta incapaz de ofrecer a la ciudadanía un proyecto que sea compartido por la ciudadanía por toda la ciudadanía y por tanto no parece que sea una iniciativa que sirva para unir a la sociedad vasca en defensa de unos objetivos comunes

es una iniciativa pensada para otra cosa para marcar posición política para dividir

y el grupo proponente nos recuerda como argumento de autoridad que el quince de febrero de mil novecientos noventa este parlamento proclamó que euskal herria tiene derecho a la autodeterminación y nos habla de la importancia de aquel pronunciamiento que supongo que se pone encima de la mesa para enganchar

y dice en este momento en que se quiere crear una ponencia que estudia la necesidad de un nuevo estatus político precisamente en este momento nos trae usted algo que quiere poner el foco en un lugar

no en cualquiera no en un lugar muy concreto y muy determinado y no desde la perspectiva del diálogo ni de la legalidad ni del acuerdo entre diferentes como el que hemos acordado hace pocos días socialistas y nacionalistas y que ha refrendado este parlamento un apunte usted hablaba de que no es necesario venir a decir

el derecho a la autodeterminación y decía ahí está el ejemplo de gran bretaña y es verdad en gran bretaña tampoco existe el derecho de autodeterminación a la constitución

el reino unido de la gran bretaña no tiene constitución por lo tanto difícilmente puede aparecer o no ese derecho

a nosotros nos gusta más remitirnos a una resolución mucho más reciente de esta cámara que se produjo el veinte de febrero de este mismo año por un acuerdo entre el grupo socialista y el grupo de nacionalistas vasco y cuyo primer punto dice textualmente

acuerda constituir en su seno una ponencia específica sobre autogobierno que evalúe el estado actual del desarrollo estatutario y sus logros y que de acuerdo con las normas y procedimientos legales

como expresión de la voluntad política de la ciudadanía representada en este parlamento una resolución para ahondar en el marco estatutario

yéndonos a aventuras autodeterministas de las que ha habido algunas pero que nunca han resultado fructíferas para este país y además tiene el valor de que es una resolución

cuarenta y tres escaños y que se impuso a un frente del no de treinta y dos votos formada por ustedes por el pp

fin en algunas cosas coinciden y no viene mal recordar también que aquella mayoría parlamentaria que optó en mil novecientos noventa por el derecho de autodeterminación

hace poquitos meses en este parlamento se aprobó por treinta y ocho votos justos prestaron ustedes los necesarios para que se aprobara porque el resto de los parlamentarios de bildu

y tampoco podemos olvidar lo que dio de sí la defensa del derecho de autodeterminación muy poquito después de haber sido aprobada en esta cámara por esa escuálida mayoría la imprescindible fue precisamente el que originó la ruptura del gobierno tripartito nacionalista

de haberse constituido ese gobierno el gobierno vasco más breve de toda la historia

precisamente por el derecho de autodeterminación y habrá que recordar también que tuvimos que ser en aquel momento los socialistas vascos los que dimos solución

como antes tuvimos que solucionar la situación de desgobierno creada por la escisión del pnv cuando era lehendakari un señor que ahora comulga con las tesis de ustedes de bildu

y después tuvimos la ocasión de ver a dónde nos condujeron los planes soberanistas

planes y consultas que eran tan populares y tan respaldadas por la mayoría de la sociedad vasca que el pnv los guardó en un cajón en cuanto llegaron las selecciones porque también se acuerdan de eso verdad y señorías lo mejor que podrían hacer quienes quieren

probablemente sea tener la autodeterminación durante mucho tiempo bajo siete llaves como alguien dijo que había que hacer con el sepulcro del cid porque no es la autodeterminación

con acuerdos entre distintos y desde luego no con imposiciónde unos sobre otros

como se ha creado la educación pública o lanbide o esas políticas sociales de las que tanto

con el pacto estatutario y con este marco de autogobierno en el que cabemos todos porque todos nacionalistas no nacionalistas populares socialistas independentistas estamos representados en este parlamento vasco y los socialistas vamos a intentar seguir prestigiando

y tratar de reforzarlo con todas las reformas que sean necesarias por supuesto y se pueden hacer además en el marco de la legalidad y sobre la base de un consenso amplio y esto que estoy diciendo suena muy parecido a expresiones que hemos oído al lehendakari en muchas ocasiones

y eso es lo que vamos a defender los socialistas a la ponencia de autogobierno porque creo que es lo que tenemos que hacer y lo tenemos que hacer por sentido de país

basado en el acuerdo suscrito por una mayoría parlamentaria como la que formamos los grupos socialista y nacionalista esa es la referencia ese es el guión por el que hemos decidido movernos los socialistas en la ponencia de autogobierno el problema es que ahora uno no sabe qué van a hacer los nacionalistas van a seguir defendiendo aquel texto en letra y espíritu o van a defender otra cosa porque

que lo dice en cada caso nos gustaría que el pnv refrendase lo que hace escasas semanas hemos aprobado en este parlamento y por eso nuestra enmienda viene a decir que el parlamento vasco reitera su voluntad de ahondar en la vía del autogobierno refrendado en las urnas

el actual estado del desarrollo estatutario y fijando desde el máximo consenso y de acuerdo con las normas y procedimientos legales esto les suena a ustedes verdad les suena el discurso del gobierno

y con el objetivo de reforzar la convivencia entre diferentes y de que el autogobierno siga siendo un instrumento para garantizar el pluralismo de la sociedad vasca y el progreso y bienestar

señora consejera hay una máxima que a mí me gusta mucho recordar y es que no se puede

no viejos del lugar sino los más experimentados del lugar así lo recuerdan

como esta y en concreto sobre la autodeterminación conceptual jurídica y políticamente y muchas voces autorizadas han centrado también el debate precisamente el debate jurídico porque creo que es importante también que despejemos desde el principio

que además de ser rechazables políticamente y eso es la democracia no se ajustan a la realidad jurídica yo creo que es importante que para que consigamos al menos intentar entendernos

y compartamos al menos de qué estamos hablando y qué son los conceptos y las posiciones políticas que ponemos sobre la mesa porque entonces sí que va a ser radicalmente imposible que consigamos avanzar hacia ningún lado

el señor pastor en el reino unido no existe constitución es la tradición jurídica constitucional

base a un acuerdo el que permite la celebración de determinada consulta remitiendo su convocatoria al parlamento escocés pero este no es el caso

lo importante que creo que es fundamental que quede bien claro y es que

no se está reprimiendo el derecho a la secesión

de ningún independentista sino que es el ordenamiento jurídico internacional o es en el ordenamiento jurídico internacional donde no existe tal derecho de secesión

tal y como va a aprobar y va a respaldar el partido nacionalista vasco no existe

el error primero y la discrepancia primera es de partida es conceptual

nada tiene que ver en el propio derecho internacional nada tiene que ver con la liquidación de un estado democrático en este caso

en un estado miembro de la unión europea el auténtico derecho

de los pueblos está perfectamente acotado como les digo en el derecho internacional en las resoluciones de la asamblea general de naciones unidas la

en los pactos internacionales de derechos humanos del año mil novecientos sesenta y seis y en el acta final de helsinki de mil novecientos setenta y cinco

todos esos pronunciamientos internacionales acotan y definen qué es exactamente el derecho de autodeterminación y dice que para hablar de derecho

se tiene que responder a dos requisitos el primero de ellos

no puede servir nunca de excusa para la ruptura de la integridad territorial de un estado democrático y el segundo de los requisitos es que el derecho de autodeterminación solo cabe

solo cabe en supuestos de situación colonial o los anexionados por la conquista dominación extranjera ocupación y pueblos oprimidos por violencia masiva o flagrante de derechos humanos

su persistencia la persistencia de bildu y del partido nacionalista vasco por seguir abanderando la autodeterminación cae por su propio

y claro mientras uno tiene la sensación de que buena parte de la ciudadanía nos ve como las vacas miran pasar al tren digo a los políticos y a los debates

en este parlamento porque mientras ellos nos piden que miremos al futuro porque mientras ellos nos piden que resolvamos sus problemas oiga que le vamos a hacer los ciudadanos quieren que resolvamos sus problemas

centramos y nos regodeamos en debates viejos y caducos legítimos para el que tenga estas obsesiones pero viejos y caducos también legítimamente opinamos otros sino que además se plantea interesadamente

enmaraña aún más la situación porque al eufemismo tradicional a las posiciones ya conocidas por ejemplo la constitución es verdad señor pastor lo ha traído usted muy bien a los posicionamientos planteados en esta cámara en relación a la constitución y al por qué al origen de la constitución de la ponencia para analizar el autogobierno

todo aquello que nos había dicho que iba a ser su planteamiento y su posición de diálogo de reflexión de búsqueda del entendimiento hoy apoya nada más y nada menos un concepto que además es equivocado de la mano de bildu como es el derecho de autodeterminación y así es imposible

ustedes están en una batalla en una lucha que a veces les lleva a estar juntos otras

pero el país la ciudadanía y esta cámara se bloquea

que no nos lleva a ningún sitio por eso es tan importante por eso fundamental que independientemente de las posiciones políticas legítimas que unos y otros tengamos intentemos establecer el debate en sus justos términos y en términos en todo caso razonables

qué quiere señor lehendakari porque es que un día nos dice una cosa y otro día nos dicen otra

a reflexionar a compartir un futuro

otras veces hablan de derecho a decidir y otras veces como reforma del actual estatuto de autonomía

necesitamos saber sería bueno que supiéramos qué es lo que realmente quiere el partido nacionalista vasco y yo entiendo que les aprietan entiendo que les aprietan

y que les llevan a una posición incómoda para ustedes pero

y de esas apreturas si es que quieren pactar con el resto si es que quieren buscar el entendimiento con el resto de formaciones políticas de esta cámara más allá de eh bildu

es que estamos dispuestos a reflexionar a debatir

estamos dispuestos a buscar el entendimiento qué más ofrecimiento podemos hacer pero tenemos que buscar el entendimiento desde unas bases sólidas sabiendo exactamente qué es lo que quieren ustedes para que por lo menos podamos decirles qué es lo que queremos nosotros

eh bildu o cualquier otra posición política más radicalizada y nosotros y voy terminando ya señora presidenta creemos de verdad profundamente y se lo he dicho en alguna otra ocasión y no voy a repetirlo demasiado aquí que es un profundo error es un tremendo error están mirando permanentemente al siglo veinte cuando el veintiuno ya empezó a andar hace mucho tiempo cuando estos debates de la autodeterminación

moderna una sociedad con unos niveles de bienestar más que evidentes una sociedad que debe de buscar una posición en europa protagonista

que estemos con estos debates de la autodeterminación de los pueblos suena cuando menos aburrido caduco y viejo señor egibar y ustedes nos retrotraen a debates del año mil novecientos noventa y usted saldrá a esta tribuna señor egibar diciendo que ya lo decíamos nosotros en el año noventa

en el siglo veintiuno como si nada hubiera cambiado desde el año noventa hasta estos tiempos y nada fuera a cambiar mañana

identitarios de una formación política o los intereses identitarios de cada uno de los que estamos aquí representados y perdemos el tren perdemos el hilo perdemos la conexión perdemos la conexión señor egibar con la realidad

termino ya antes lo he dicho pero quiero formularlo de una manera más concreta

a quienes plantean proyectos de ruptura a quienes plantean proyectos de autodeterminación es que expliquen con sinceridad sus consecuencias qué pasa el día después qué pasaría el día después cuál es su día después

una deriva que les obliga a escoger que les obliga a los ciudadanos a tener que optar a tener que renunciar a una parte de lo que ahora tienen porque eso es lo que ustedes plantean a los ciudadanos que renuncien que opten

a elegir lo menos que deberían hacer

los riesgos los costes y las consecuencias de esa hipotética elección de forzarles a elegir y creo que es que un responsable político o que un político responsable debe de hacer desde luego es lo mínimo que se merece un debate parlamentario y es lo mínimo

agosto del dos mil once siglo veintiuno

congreso de los diputados se sitúa reforma constitucional

en una reforma constitucional exprés ya saben ustedes para qué para modificar

el partido nacionalista presenta una propuesta de modificación de la constitución española

que texto era el que hoy presenta bildu agosto

el texto que hoy presenta bildu porque bildu vuelve a copiar el texto del noventa

por cierto uno de los que votó entre otros mario onaindia presidente después de los socialistas votó la proposición

como para ustedes no existe nada que no exprese diga la constitución española o mejor dicho

pues el partido nacionalista vasco presentó la modificación propuesta de modificación

hoy tiene otra responsabilidad el partido nacionalista vasco tubo una posición clara y presentó la propuesta de modificación de la constitución española pero las razones que nos traen hoy aquí a debatir esta cuestión son otras podemos discutir no tenemos mucho tiempo

ya vamos a tener oportunidad en la ponencia de autogobierno

cuando a mí se me transmite la posibilidad de que con motivo del veinticuatro aniversario

aniversario de aquella resolución la oportunidad de presentar una propuesta ratificación de lo que entonces se aprobó yo traslado al señor urizar le digo oye pues no veo conveniente que me traslades a aquel debate

pensando más en vosotros en bildu porque

igual que el partido nacionalista vasco y euskadiko ezkerra

herri batasuna se ausentó de la votación hubo un debate y les invito a que lean y relean el debate

que yo hoy sí quiero incorporar aquí porque yo dije les comenté que lo mejor sería no debatir eso en este momento

alguno de ellos que no está presente me dijo error por nuestra parte el haber presentado esa iniciativa no por lo que tú piensas sino que os va a servir a vosotros

con una aceptación del texto si el texto es nuestro después de este parlamento

me voy a las claves porque dicen ha habido dos hitos dice bildu

quince de febrero y treinta de diciembre de dos mil cuatro en la primera

repito no eusko alkartasuna pero sí herri batasuna y en la segunda eusko alkartasuna vuelve a votar a favor quiero decir el treinta de diciembre de dos mil cuatro la propuesta de nuevo estatus político y

tres votos a favor tres votos en contra resultado cero

pero vamos a los porqués porque también al partido socialista nada de esto existe en mil novecientos setenta y cuatro en el congreso de suresnes se aprueba el principio del derecho de autodeterminación de los pueblos y en el año mil novecientos setenta y seis el partido socialista ratifica el principio sí evoluciona sin límite así os va así os va

tiene de portavoz al parlamentario iñigo iruin

dice que estamos analizando el derecho que estamos desnaturalizando desitsuratzen que hemos incorporado sucedamos como los derechos históricos

y aboga por esa expresa reforma constitucional y por supuesto contrapone al estatuto de autonomía lo que era el estatuto

aquí veteranos o no son más jóvenes pero cuando se constituye este parlamento también hay una asamblea de parlamentarios

convocados por telesforo monzón y con juramento incluido pero bueno la vida sigue y ocurre que también en ese mismo debate se dirige a eusko alkartasuna y dice

y lo hacemos utilizando las mismas palabras que su secretario general ha dirigido al partido nacionalista vasco

y de la reforma del marco legal es posible un planteamiento correcto del derecho de autodeterminación cualquier otra postura es un ejercicio de malabarismo

señor urizar malabarismo y sigue

residenciarse la posible negociación y son las conversaciones de argel porque venimos después del fracaso de argel en el que efectivamente el partido socialista obrero español y

hablan del derecho de autodeterminación no voy a decir que negocian hablan del derecho de autodeterminación y para rematar la cuestión se dice en aquel momento a los partidos que votamos

a lo que puede ser su tratamiento en el ámbito institucional y la legitimidad y la defensa de todas las ideas políticas expresadas democráticamente se nos contesta lo siguiente

porque hoy nuevamente bildu habla pero sortu sortu se camufla en bildu no baja a tribuna

ningún parlamentario de sortu

porque se dice lo siguiente los partidos autoenmendantes tal pretenden al parecer de acuerdo con su punto cuarto

sea el de las instituciones y en concreto la de este parlamento

así refiere en su intervención nosotros no creemos en tales afirmaciones en cualquiera de los casos tienen ustedes la oportunidad

consigan efectivamente inicien efectivamente negociaciones con el estado español para el reconocimiento del derecho de autodeterminación

pero si no son capaces si no tienen voluntad política como se deduce como se colige del contenido de la autoenmienda no tienen ningún derecho a protestar porque a través de otras vías no institucionales se pueda precisamente buscar la solución a este problema en esto consiste precisamente

y es que hay una relación directa entre el derecho de autodeterminación y la consecución de la paz esta fue la razón

qué ha ocurrido veinticuatro años después o veintiuno o veintidós años después que esa estrategia político militar que ha sido clausurada desaparece

permanente que eta al parecer alumbraba en todos los procesos negociadores

en off la política se queda a oscuras

resetear políticamente y decir vamos a presentar una proposición no de ley

también existían otros tres puntos y yo le decía al señor urizar

y efectivamente nos ha traído al debate zergatik etorkizunari begira eta

y vamos a estar en esa ponencia discutiendo de estos y otros temas evidentemente no podemos acotar los debates

lo mismo que este texto cuya paternidad no se puede discutir en todo caso entre el partido nacionalista vasco

este texto ha tenido un recorrido ha sido presentado por el partido nacionalista vasco como una propuesta de modificación de la constitución española

nacionales españoles entienden oportuno en esta reflexión abierta sobre modelo territorial

dentro de la estructura política del estado español por lo menos la oportunidad está abierta y nuestra iniciativa no fue ni del siglo pasado solo

y repito agosto de dos mil once eskerrik asko egibar jauna

maneiro la verdad es que el que haya entrado ya amenazando directamente denota miedo

de que la voluntad mayoritaria de este pueblo decida avanzar como lo está haciendo el pueblo catalán y el único recurso que le queda es la amenaza la amenaza que está vez sí nos hemos librado nosotros es la única vez porque han amenazado a todos los restos de las formaciones políticas

es curioso que algunas referencias a lo que hace canadá

como la ley de claridad que es una ley canadiense pero

pero no dice nada cuando el tribunal superior de canadá estima que si la mayoría de los quebequeses tienen derecho tienen derecho o deciden

que el gobierno canadiense está obligado a sentarse a negociar de eso no habla las referencias son las que nos interesan

el articulo numero uno del pacto internacional de las naciones unidas de derechos civiles y políticos sí habla del derecho de autodeterminación y el articulo uno

económicos sociales y culturales también habla del derecho de autodeterminación estaba diciendo que en ningún sitio aparece aparecer sí aparece y también hay constituciones

como la de portugal la de estonia la de irlanda eslovenia eslovaquia y lituania que reconocen ese derechos entonces

no es verdad señor pastor siempre intenta situar como antitesis los derechos sociales y el derecho

totalmente compatibles totalmente y es más en las últimas elecciones así lo presentamos nosotros teníamos tres líneas dos

y la sociedad ha respondido en positivo es más si extrapolásemos los resultados de las ultimas elecciones a esta cámara

representantes que apoyasen el derecho de autodeterminación de los que hay ahora quizás el problema lo tienen ustedes no nosotros y desde luego el argumento de la cantidad de votos me parece

le traslado una pregunta cambiará su opinión y su posición si hoy aquí salen cuarenta y ocho votos a favor de esta propuesta no debería señor sémper

la realidad jurídica no puede ser nunca argumento para frenar las aspiraciones de la mayoría de la ciudadanía nunca nunca las leyes se adaptan a lo que dice la mayoría de la ciudadanía es así de claro

y desde luego ejemplos de que voluntad política sí ha habido en el pasado

los hay los hay cuando europa del este entro o se unió a la europa occidental eso era voluntad política

también hubo voluntad política cuando chequia y eslovaquia decidieron de manera democrática

y también hay voluntad política cuando el reino unido cambia su propia legislación para hacer posible que escocia

para responder a lo que dice la mayoría de la ciudadanía y desde luego debates estratégicos síes verdad a usted no le parecerá este debate estratégico quizás sí le parezca estratégico un tema que traen ustedes mañana que es de los tulipanes esa es la diferencia nosotros llevamos a las elecciones este tema y recogemos el apoyo del pueblo

y quizás recojan más votos eta egibar jauna bukatzeko

sí gracias presidenta que quede claro que no queremos fusilar a nadie antes de empezar lo que yo he dicho es que si efectivamente quería decir esto

si efectivamente lo que digo yo el lehendakari nuestro querido lehendakari

si hoy vota a favor del derecho a la autodeterminación lo que digo yo es que esto debería tener consecuencias políticas es decir

hablaba el señor sémper de triple salto mortal yo creo que es un asunto lo suficientemente relevante y grave como para que los demás partidos políticos caigamos en la cuenta

y por lo tanto digo yo ojo tenemos a un lehendakari que hace tres semanas a los miembros de la ponencia que no tocáramos el derecho a decidir que no habláramos de ello y sin embargo tres semanas después se suma a la propuesta de eh bildu

y de lo que después venga y ante esto digo yo consecuencias políticas legalidad vigente democracia pero no estoy preocupado de hecho luego he dicho que tranquilidad absoluta porque esto no va a tener consecuencias prácticas esto no va a llevar a ningún lado más que al enfrentamiento

pero este debate no va a llevar a ningún lado no tiene consecuencias prácticas más allá del enfrentamiento más allá de las guerras fraticidas entre nacionalistas vascos esto no interesa a la ciudadanía dedíquense a lo importante

a salir de la crisis económica a crear empleo dedíquense a esto esto es lo que los ciudadanos quieren no que ustedes se enfrenten para ver quién defiende más o menos o cómo el derecho a la autodeterminación que efectivamente no existe en ninguna parte del mundo ya digo esa es la amenaza que planteaba upyd

hoy y vota esto hoy los demás partidos políticos también ahora o más adelante tendremos también que utilizar nuestro poder político también exigirle a usted pues que diga que no está de acuerdo con esto evidentemente lo sabemos perfectamente las leyes pueden cambiarse la constitución española puede cambiarse el estatuto de gernika puede cambiarse no solamente puede cambiarse debe cambiarse

respetando la legalidad vigente tenemos una ponencia de autogobierno en marcha no tenemos ningún problema en hablar de todos esos asuntos pero respetando la legalidad vigente modificación de leyes sí por lo tanto pero para que haya más igualdad

para que haya más bienestar para eso hay que modificar la constitución española el estatuto de gernika o la ley de territorios históricos no para darles la razón a ustedes

no para que haya un enfrentamiento mayor entre los ciudadanos no queremos más enfrentamiento no queremos más fronteras queremos menos fronteras que vivimos en el siglo veintiuno

para esto hay que modificar las leyes para esto tiene que servir un parlamento para esto tienen que servir los debates para ver qué hacemos para que la ciudadanía pueda vivir mejor ese es el objetivo en el siglo veintiuno están ustedes planteando levantar nuevas fronteras sacarnos de la unión europea sacarnos del euro vivir peor un disparate esto es lo que ha sido el debate de hoy un disparate que no sirve para nada más que para que la ciudadanía

cíclico y afortunadamente hoy el señor egibar no nos hablado de la conspiración mundial contra el pnv lo cual le agradezco pero todo lo demás

es verdad que se propuso por parte de ustedes una reforma de la constitución y se hizo en el momento que se produjo aquella modificación express de la constitución de lo que he de confesarle que yo no me siento especialmente orgulloso pero si ese es el problema que los socialistas hemos propuesto una reforma del constitución para dar encaje a un modelo territorial de carácter federal súmense

dentro de un orden y con un carácter incluyente y desde luego de cierta efectividad

y como vimos que nos habíamos equivocado cambiamos y crea usted que le agradezco infinito

de eso nos ocupamos nosotros ustedes preocúpense de cómo les va a los ciudadanos con ustedes con este gobierno

de cómo ven que tengamos que pagar de las arcas públicas treinta millónes por errores de ustedes de cómo se soluciona un paro que sigue creciendo día tras día con más fuerza aquí que en ninguna otra zona de españa

les compete y que nos parece bastante importante y luego me extraña mucho en este debate que ustedes mantienen sobre este asunto

hubiera salido aquí y hubiera dicho no estos temas aquí no se discuten estos a la ponencia de paz y convivencia que sirve para todo parece que la del autogobierno no porque ustedes podían haber usado el mismo argumento

constituida al efecto con un amplio acuerdo con un pacto además suscrito expresamente con ustedes remítanse a la ponencia

del autogobierno de su profundización de su mejora de su reforma y de sus modelos pero no

usted tenía el texto suyo es verdad que plantean estos señores a modo de señuelo

de febrero validado por ustedes por el propio lehendakari y por el gobierno con palabras textuales

o parece que va a elegir uno de los dos y el otro lo deja de lado

porque a qué vamos a jugar en esa ponencia a acabar planteando la tesis que estos señores al menos no engañan que han dicho en muchas ocasiones que quieren plantear

o no o no dedicamos simplemente a entretenernos un rato para que esto señores no den guerra durante un tiempo

porque en este país señores de bildu y señores del pnv hay mucho nacionalista que es independentista y también mucho nacionalista que no lo es por lo menos ahora de momento

habrá que intentar como mínimo que toda esa realidad que constituye euskadi se sienta mínimamente reconocido por sea cual sea el modelo por el que entre todos apostemos y con este tipo de actuaciones yo entiendo que son legítimas desde luego no se consigue ese objetivo

exactamente el contrario exactamente el contrario y probablemente lo aprueben ustedes con una mayoría de cuarenta y ocho votos como dice el señor

garantía de democracia pero el hecho del ejercicio del voto no garantiza el uso que se dé de él y sin hacer comparaciones por la fuerza de los votos al gobierno llegó por la fuerza de los votos por lo tanto los votos además

valores es decir la mera aplicación aritmética de una realidad no constituye por sí sola la garantía de que eso se ajuste a lo que la sociedad necesita

al menos al tenor de los discursos oficiales que hacemos socialistas nacionalistas populares necesita de mucho acuerdo de mucha política inclusiva de mucha colaboración

de mucho de todo eso y un poquito menos de esto que es una aspiración legítima de ustedes a ratos es verdad

a colación o no y de ustedes pero hay otra parte importante de la sociedad que tiene otras habrá que intentar conjugarlas y que nos sintamos todos relativamente cómodos o relativamente incómodos como ustedes prefieran y eso hoy lo estamos pudiendo empezar a destrozar un poquito más

cuando le escucho que tiene usted muchas cuentas pendientes porque

que respira por la herida y eso no suele ser bueno porque dificulta el entendimiento porque oyéndole hablar

no es si se copia se deja de copiar no es si uno lo dijo antes si otro lo dijo después

si argel si chiberta que no es eso

no se trata de eso al menos yo creo que no estamos aquí para eso estamos para otras cosas y claro usted ha dedicado

el tronco de su intervención a saldar cuentas con estos señores y hablarnos

decía usted no solo es del siglo pasado no y del anterior también es verdad

al menos loable la terquedad pero la pregunta es si esa terquedad beneficia en algo al conjunto de la población

facilita o no el entendimiento porque independientemente de cuándo la presentaron por primera vez

es que la última decisión compartida en este parlamento y que además constituye una ponencia para hablar de autogobierno hoy se ve superada por esta declaración política que ustedes hacen

su defensa de la independencia de euskal herria desde ya qué debate se va a producir porque yo recuerdo que en una sala en el despacho de su grupo parlamentario

con usted presente y algún otro dirigente con representantes de mi partido ustedes nos hicieron un planteamiento muy claro y muy concreto primero

diagnóstico del recorrido del estatuto de autonomía de lo que ha supuesto para euskadi y de lo que podría haber supuesto diagnóstico de transferencias pendientes llamemos a expertos en derecho autonómico o en la realidad en la que nos movemos políticamente para que nos den su visión

después compartamos diagnóstico y después fases de propuestas si ustedes hoy ya nos están diciendo cuál va a ser su propuesta para qué nos vamos a sentar en esa ponencia de autogobierno

de independencia hoy formulado a través de su voto favorable a la autodeterminación que como creo que ha quedado bien claro

materialmente imposible de aplicar a euskadi porque yo entiendo que usted señor urizar el reino unido no tiene constitución vale pero que no escuche pero que no escuche

pero se lo he dicho con dos premisas con dos conceptos

segundo aplicado a países que hayan sido invadidos o que sean objeto de opresión por parte de un país invasor

si usted cree que euskadi es un país oprimido seríamos sin duda sin duda como dijo salvador armendáriz probablemente el único país oprimido del mundo el único

veranean tanto en el país opresor pero lo importante

se empeñen en dar patadas al entendimiento se empeñen en desplazarnos a quienes estamos dispuestos a buscar el entendimiento empujarnos de su lado

lo lamento profundamente de verdad es triste y es preocupante que ese sea el horizonte que usted nos planteen la patada al entendimiento la patada al diálogo

ya nos están diciendo qué es lo que van a defender y la pregunta es por qué tenemos que renunciar a nada por qué tenemos que renunciar a parte de lo que somos

que es construir euskadi juntos desde el entendimiento desde las renuncias parciales para buscar esos puntos de encuentro a través de los cuales poder seguir avanzando

es imposible que nos acerque usted sabe que la independencia es imposible que nos acerque y persisten

nuestro futuro el futuro de euskadi en mi opinión en nuestra opinión es juntos es avanzar unidos buscando lo que nos

y usted permanentemente se empeña en buscar lo que les une con eh bildu para lo cual tiene absoluta legitimidad pero aclárense primero porque si no será difícil

o su obsesión es para saldar viejas cuentas también llegar a un acuerdo con bildu o competir con bildu a ver quién es más independentista ustedes sabemos que lo son

en la definición que se incorpora como punto que se va a someter a votación

este derecho reside en la potestad de sus ciudadanos

su estatus político económico social y cultural bien dotándose de un marco propio o compartiendo en todo o en parte

pueblos aquí no hay un escenario prefijado no hay un escenario de llegada se trata de un principio democrático y hacer que la opinión libre y democráticamente expresada tenga algún valor

pero en todo caso no desde un ejercicio unilateral que tendrá que ser negociado esa es la definición que con o sin constitución

vemos que en el mundo que nos rodea bien sea en canadá o sea reino unido irlanda o sea reino unido escocia también

o la propia reunificación de alemania es un principio en vigor segunda cuestión que podría haber aplicado el principio establecido con respecto a la ponencia de paz y convivencia

creo que con buen criterio establecimos habida cuenta del boicot que existe con respecto a esa ponencia que no íbamos a tratar temas en pleno

su tratamiento en ponencia no es el caso pero sí quiero adelantar también a eh bildu porque ya veo su capacidad y su batería de iniciativas por dónde van en el intento al parecer de descolocar o

de alguna forma intranquilizar al partido nacionalista vasco estos temas se tienen que tratar en la ponencia en la fase de diagnóstico posterior de propuestas

y hoy este texto que es nuestro evidentemente por lógica y coherencia vamos a votar a favor

me fijaba mucho en el pasado no este parlamento tiene su memoria también yo este debate lo seguí desde esa tribuna

pero he seguido algunos debates y protagonizado también algunos otros pero el partido nacionalista vasco tiene una memoria memoria política histórica también

para saber exactamente cómo tienes que afrontar el futuro y no sujetar todo aquellos al reciclaje al compostaje ideológico y a la evolución

o dejé de decir ya no tengo nada más que añadir y a esa reflexión que al parecer usted

será moderna pero cursi a la vez me dice usted tal el pasado pasado usted con lo que ha pasado en este país me hace esas reflexiones con lo que ha pasado en este país

usted me imputa a mí qué tipo de responsabilidad con lo que ha pasado en este país con la combinación estratégica que ha habido en el pasado reciente por qué sale eusko alkartasuna y no sale sortu a la tribuna también a hacer su propia reflexión

y hay otra cuestión termino usted dice

quiere entenderse con nosotros o no díganos

el reconocimiento de un sujeto político no existe porque lo dice usted

habla de pueblo vasco euskal herria el adicional dice o no dice que la aceptación de este régimen de autonomía no supone la renuncia

que necesariamente habrá que actualizar estamos hablando de eso

si usted me dice que las aspiraciones del pueblo vasco representado en esta cámara en tres de los siete territorios aunque seamos el setenta y tres por ciento de la población

tienen un límite que es su pensamiento y el pensamiento del partido socialista si no tiene recorrido más allá eso sabe qué es eso es derecho a veto nosotros queremos

la ciudadanía vasca decida y por supuesto negociar sus consecuencias haciendo que la legalidad se adapte